eta guzti hau elkarlanean publikoak eta pribatuak beti bezala el centro de fabricación avanzada en energías eólicas es una infraestructura que responde al objetivo marcado en el plan de industrialización del gobierno vasco

hacia un estadio de competitividad industrial que se ubique en el entorno internacional

y plantea la puesta en marcha de una estrategia transversal de manufactura avanzada que incluye con el impulso de nuevas estrategias la validación

y las técnicas de fabricación asimismo este plan apoya la diversificación y la especialización del tejido económico hacia nuevos sectores de oportunidad sectores en línea con la estrategia de especialización inteligente del país la estrategia ristres que incorpora los objetivos de desarrollo tecnológico e industria en el ámbito de la energía también en euskadi

en este ámbito eólico la estrategia plantea apoyar a empresas líderes para el desarrollo de una oferta competitiva de país por tanto

en el sector eólico responde bajo el paraguas del plan de industrialización tanto a la estrategia de manufactura avanzada

pregunta nace de mi preocupación por la euskadi real por la euskadi de las personas que es la que

a su gobierno y es que euskadi no va bien de hecho mientras que algunos indicadores mejoran en el resto de españa aquí no aquí empeoran estamos peor

que cuando ustedes empezaron a gobernar nuestra economía no arranca el paro aumenta mientras que en otras partes baja hay menos personas trabajando hay jóvenes que abandonan nuestro país buscando oportunidades en otras partes

emprendedores que no encuentran ayuda suficiente para poner en marcha sus nuevos

más personas que han agotado el subsidio de desempleo y se quedan sin recursos

y soluciones a las difíciles y a veces dramáticas circunstancias que viven nuestros ciudadanos y ciudadanas es la primera obligación la prioridad absoluta de los gobiernos por el suyo y los socialistas estamos dispuestos a ayudar para atender estas circunstancias por eso firmamos con ustedes un amplio acuerdo para poner en marcha medidas concretas con las que combatir el desempleo y ayudar a las empresas acordamos movilizar

en tres años sin embargo lehendakari usted y su gobierno presentan de forma periódica planes en papel planes llenos de promesa pero que acaban en los cajones a la espera de la siguiente rueda de prensa

no pueden esperar el año dos mil trece fue un año perdido y ahora no nos puede pasar lo mismo usted cuenta con mi apoyo y el de mi grupo pero para pasar a la acción ya no es hora

qué actuaciones de choque va a desplegar y con urgencia su gobierno

no pueden acceder a un puesto de trabajo en nuestro país eskerrik asko lópez jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakari jaunak dauka hitza

luego si es el caso me centraré en algunas de las consideraciones que usted ha planteado antes de formular la pregunta que se refleja en su pregunta también escrita

insistiré en este momento en que el empleo y la reactivación económica son la prioridad entre las prioridades de este gobierno señor lópez por mucho que a usted le pese

no sé si usted lo tuvo pero nosotros tenemos un programa tenemos unos planes tenemos unos compromisos y las actuaciones que estamos llevando acabo están recogidas en este documento en este documento que es un compromiso con el empleo y la reactivación económica hablamos de una estrategia no de acciones urgentes coyunturales y cortoplacistas una estrategia para tres años con una dotación como usted ha dicho sí de seis mil cuatrocientos setenta y cinco millónes de euros usted sabe que en enero se remitió a este parlamento el plan de empleo sabe que el presupuesto dos mil catorce

con su identificación y su importe exacto son ciento treinta y ocho partidas presupuestarias y supone una inversión de doscientos cincuenta y dos millónes de euros

lo planificado vamos a aprobar cuatro programas de actuación un programa de promoción de empleo local en colaboración con los ayuntamientos un programa de formación para personas desempleadas con compromiso de contratación

y un programa para centros de empleo y empresas de inserción esto es lo que vamos a hacer ya en las próximas semanas beraz ez dut errealitatea ezkutatu eta horren arabera jarduten dugu

hobea izango da hala espero dut eta horretarako lanean ari gara desde el primer momento he insistido dos mil trece y dos mil catorce van a ser años duros lo he dicho

al que usted se refiere en su pregunta también tiene tres indicadores las personas inscritas en lanbide el único que usted pueda tomar como referencia el segundo es la afiliación a la seguridad social que ha crecido en marzo

dato positivo señor lópez y el tercero es el número de contrataciones que también ha crecido en marzo en un doce por ciento dato positivo señor lópez el empleo ha crecido en marzo aunque no en la medida que permita responder a los nuevos demandantes

y esta creo que es una valoración equilibrada de la realidad más de la que usted ha hecho eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna lópez jauna zurea da hitza

sí datos negativos señor lehendakari el empleo crece en toda españa el desempleo desciende en toda españa aquí no aquí empeora y gravemente

pero tener un programa y mil planes no es lo mismo que cumplirlos de hecho ustedes

han tenido ya esa han accedido ya a esa primera experiencia gracias a los programas del gobierno vasco sabe que muy pocos ustedes esta misma semana ha presentado el plan de internacionalización

solo una nueve para el año que viene y cincuenta y nueve para el dos mil dieciséis por qué por qué es año electoral es que euskadi y las personas pueden esperar tanto tiempo usted prometió ahorrar más de doscientos millónes en empresas públicas y entes autónomos pero lo que ha hecho de verdad es quitárselos a los programas de formación

ese es su camino para ayudar a los desempleados negarles la formación el dieciocho de octubre del año pasado hace ya seis meses

de larga duración a día de hoy ni uno solo contratado dónde están los veinte millónes que se habían destinado para ello podía seguir poniendo ejemplos de anuncios

pero yo no le critico por lo que hace sino por lo que deja de hacer muévase traiga su gobierno al mundo real de las empresas de los jóvenes de los parados deje de enredarse en otras cosas y póngase a trabajar para liderar un gran esfuerzo colectivo de toda la ciudadanía vasca porque
de papel solo llenan páginas de periódicos pero no dan ni empleo ni ayudan a las empresas eskerrik asko lópez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

usted tira mucho de titulares de determinados medios de comunicación y sin embargo le aconsejaría que hablara mucho más con los agentes económicos y sociales implicados en todo caso desde luego que los problemas existen somos autoexigentes y no somos autocomplacientes mire en junio de dos mil nueve llegó usted al gobierno y había ciento dieciséis mil personas paradas

su balance cincuenta y tres mil personas paradas más en tres años y medio yo no voy a hacer demagogia nik eredu bat dut

le aconsejo que mire usted también el grado de cumplimiento de los acuerdos

la situación económica es de emergencia nacional y nos demanda una acción inmediata no podemos perder el tiempo tenemos que afrontar la crisis de verdad tomando medidas de verdad asumiendo los problemas

octubre de dos mil doce el lehendakari campaña electoral así se presentó usted ante los vascos asegurando que su llegada

de un nuevo tiempo para euskadi así convenció a una parte de los vascos para auparse lehendakari desde entonces han pasado

antes de la recesión lehendakari el país vasco contaba ya con una alta renta per cápita un elevado nivel de industrialización una buena dotación de capital humano una menor tasa de paro estructural y una tasa de apertura exterior que prácticamente duplicaba a la media de las demás regiones en el último año lehendakari la caída de la economía en el país vasco se cifró

uno coma nueve por ciento siete décimas más que la del conjunto de españa que fue del uno coma dos por ciento los últimos datos de paro en euskadi se elevan a ciento setenta y ocho mil ciento cuarenta y ocho personas

recibieron la renta de garantía de ingresos que va incrementándose

que no hay recursos suficientes y la pregunta es lehendakari qué hace su gobierno para sentar a empresarios y sindicatos y alcanzar

hoy después de año y medio realmente cree que se ha iniciado un nuevo tiempo en euskadi bajo su mandato ha tomado como decía entonces medidas de verdad
asumiendo los problemas de verdad muchas gracias eskerrik asko quiroga

a ofrecer datos comparados relativos entre euskadi y el

solicita la adopción de medidas al gobierno vasco y usted me cita entre los datos comparados datos coyunturales también del mes de marzo le recuerdo que también en dos mil trece el año pasado el mes de marzo fue el peor mes del año y se cerró el año como he respondido también en la pregunta anterior mucho mejor

en cualquier caso le voy a citar las diez medidas estructurales que hemos adoptado como parte de una política económica integral y de futuro rigor presupuestario para cumplir el objetivo de déficit con las aportaciones que hemos hecho al ministerio del gobierno español en el uno coma uno por ciento

mejora del rating de solvencia incremento de la inversión extranjera segunda comunidad en inversión extranjera del año pasado dos mil trece índice de producción industrial en indicadores positivos

de la media europea señora quiroga tasa de creación de empresas positiva

somos con navarra la única comunidad del estado calificada con innovación notable entre ciento noventa regiones europeas mejora de la protección social

veinte veces más que la media española y además aplicamos un plan de empleo para responder a esas ciento setenta y ocho mil persona

este plan está dando resultados hoy hay más contrataciones hay más contrataciones y más afiliados a la seguridad social y vamos a seguir adoptando medidas invirtiendo doscientos cincuenta y dos millónes en programas de empleo beraz hilabete

gracias señora presidenta lehendakari yo no le he hecho una comparación con el resto de españa eso se lo ha hecho el señor lópez que le ha reconocido que efectivamente las cosas van mejor en el resto que aquí yo le hablo de los

que están en paro que necesitan una solución

está haciendo vamos a la producción legislativa será difícil encontrar una legislatura

un ejemplo de esos planes que ustedes nos presentan casi cada mes diecisiete de octubre de dos mil trece aprobó su gobierno a través de lanbide ayudas para promocionar el empleo mil quinientos euros para cada iniciativa empresarial unos meses después los perceptores

esas ayudas yo le hablo por ese pacto social por el empleo es que tenemos un problema lehendakari un problema que usted no está abordando

que es la conflictividad laboral y usted sabe que eso es fundamental para la creación de empleo estamos en una situación como usted bien definió

y eso requiere de medidas reales de ponerse

sobre todo crear cooperación y mire sus declaraciones últimas lo que

además de hacer bien poco por asumir la realidad camufla esa inactividad fomentando el desencuentro seremos ha dicho usted y somos un problema para españa brillante contribución al esfuerzo común a la cooperación necesaria a la responsabilidad política que usted debería ejercer es verdad que va en su adn lehendakari pero eso no es lo que necesitamos los vascos en este momento que se quede y recuerde sus palabras en campaña electoral no podemos perder el tiempo lehendakari trabaje por un acuerdo social por el empleo y ahí estaremos los populares

haber empezado por que su intención hoy era hablar de las declaraciones en relación a lo que fuera el debate en el congreso de los diputados

y lo que yo dije sobre ese particular y no sobre la crisis económica haber empezado por ahí que esa era su intención en el debate de hoy mire

y soy también el primero en defender el modelo vasco de desarrollo económico ese modelo vasco que estamos trabajando con todos los agentes sociales y es radicalmente falso

a que no estemos trabajando por el pacto social por el empleo saben la mayoría de los sindicatos lo que estamos haciendo saben también las organizaciones empresariales lo que estamos haciendo

mire mi actitud no es complaciente es exigente sé que tenemos mucho camino por recorrer pero no acepto una visión catastrofista una visión siempre crítica y siempre negativa que nunca ofrece alternativas señora quiroga la verdad completa es que en euskadi se está creando empleo

en dos mil trece hubo más personas trabajando que en dos mil doce y en dos mil catorce habrá más personas con empleo que el pasado año en euskadi tenemos un modelo serio y riguroso que funciona no el modelo que usted representa y que se aplica en españa

gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor lehendakari

se ha conocido que los consejeros de salud y de seguridad del gobierno vasco han recibido clases de oratoria es decir clases para expresarse mejor estas clases de oratoria

a razón de más de trescientos euros la hora además hemos sabido que este contrato se adjudicó a la empresa de forma directa sin concurso ni publicidad ni concurrencia esta empresa es propiedad del señor

entre otros actual director del deia ex director de etb y ex responsable de comunicación

en fin una persona muy cercana al partido nacionalista vasco un amigo suyo señor lehendakari estas cuestiones merecen una explicación

por estos consejeros cursos para hablar y expresarse mejor en público que los cursos

los ciudadanos vascos el precio de estos cursos más de trescientos euros la hora y que el contrato haya sido adjudicado a una empresa amiga

señor maneiro que en la era de la formación continua en la era del aprendizaje

que se ideó precisamente para atender las necesidades formativas

que en un momento en el que se asume de modo generalizado la idea de que

que se precie de tener un plan de gestión a de complementar el plan de gestión con un plan de formación integral y permanente desde la cúpula hasta la base de la plantilla permita adaptar y actualizar las competencias las destrezas las habilidades de todos sus integrantes que en un contexto así la única organización cuyos cuadros directivos no pueden actualizar sus destrezas sus competencias y sus habilidades sea

sea este gobierno francamente me sorprende y no lo comparto con respecto a las

los contratos menores no la ley vasca la ley española dice claramente que se adjudicarán

a cualquier empresario que tenga capacidad de obrar y que esté habilitado profesionalmente para desempeñar las funciones encomendadas por tanto legalidad

la valoración económica que a usted le parecía excesiva está homologada yo he mirado por curiosidad

que fueron muchos que se impartieron en la pasada legislatura con similares contenidos y he visto que están en la línea de lo que se cuece en el mercado

yo no he hablado de ilegalidad por cierto puede ser perfectamente legal pero a nosotros nos parece éticamente absolutamente rechazable

rechazable que además se abonen unos cursos que usted dice de formación continua y que son para que dos consejeros del gobierno vasco que se supone debían venir aprendidos de casa puedan expresarse mejor y hablar en público mejor

y usted habla de formación continua yo creo que los consejeros de este gobierno y de cualquier gobierno tienen que venir aprendidos de casa estamos hablando de trescientos euros la hora estamos hablando de cinco mil euros estamos hablando de un hecho relevante hay otros asuntos más importante que este seguro

ahí están los datos del paro ahí está la situación económica efectivamente pero esto es un asunto muy sensible para los ciudadanos que se pague trescientos euros la hora

en público este es el asunto que se paguen esas cuantías y que además la empresa adjudicataria sea una empresa de un amigo del partido nacionalista vasco esto nos parece absolutamente

nos parece que es una corruptela nos parece que es una corruptela seguramente hay más seguramente hay más y seguiremos haciendo preguntas pero esto nos parece un hecho muy relevante y usted encima lo justifica como lo justificó en su momento el señor a nosotros nos parece absolutamente injustificable que se paguen estas cuantías a dos consejeros para hablar en público

que no estaban lo suficientemente preparados cuando el lehendakari incorporó a estas dos personas al gobierno porque justo después se les tiene que enseñar a hablar

esto es lo que usted llama formación continua nos parece un abuso inaceptable y además llueve sobre mojado otros gobiernos han hecho cosas parecidas

hemos sabido que la propia directora de emakunde ha recibido cursos para aprender

a nosotros nos parece absolutamente injustificable nos parece

eskerrik asko legebiltzarburu andrea los cursos si usted ha atendido bien
y ha leído con detenimiento la información que se la ha suministrado no eran de oratoria eran de habilidades comunicativas que es algo completamente distinto bien

al coste de esos cursos los costes insisto están absolutamente

con el mismo tipo de cursos con este tipo de destinatarios estamos hablando de cuadros directivos de grandes organizaciones usted ha planteado muchas cuestiones en relación mire

es una práctica habitual en todas las organizaciones públicas de nuestro entorno en todas la legalidad es absolutamente incontestable

y lo de que hay que venir aprendidos pues está muy bien

pero hombre aquí en la cámara hasta donde yo sé se imparten cursos destinados a los que ocupan escaños sobre inglés y euskera aquí no hay que venir aprendidos solamente hay que venir aprendido al gobierno vasco mire a todas las organizaciones hay que venir aprendido de hecho en las organizaciones públicas para eso se idearon hace mucho tiempo las oposiciones

precisamente medían el mérito y la capacidad y solamente quien acreditaba mérito y capacidad estaba en condiciones de integrarse en una organización pública pero eso no quita para que a pesar de que se acreditan mérito y la capacidad en el ingreso se organicen muchos cursos de formación continua de aprendizaje a lo largo de la vida

y un curso de habilidades comunicativas es un curso que viene bien

y haya una mejor interrelación interna entre las estructuras jerárquicas de la estructura muchas gracias eskerrik asko

une honetan ez bakarrik espainiar estatuan baita europa osoan zehar ez bakarrik erresuma batuan comienzo por lo tanto señor urizar por el contexto porque vivimos

negándose a este nuevo tiempo político que es una realidad un tiempo que nos exige transparencia y claridad

con la participación de todos los grupos parlamentarios de la cámara este es el marco en el que todas las fuerzas políticas vamos a poder plantear nuestras propuestas y proyectos

del autogobierno es una asignatura pendiente no es una asignatura cualquiera es troncal es fundamental para el futuro de nuestro país el partido nacionalista vasco se presentó ante la sociedad con un programa electoral muy claro

político y hemos adoptado el compromiso de propiciar su formulación la presente legislatura ya me he referido a lo que fue la conferencia de euskadi dos mil veinte la contextualización de cómo querría yo que euskadi fuera en el año dos mil veinte que eso no niega

y participamos de la metodología que la misma ha establecido para su avance este es el lugar donde se va a debatir esta cuestión no porque lo diga yo sino porque lo ha decidido este parlamento y ustedes parlamentarias y parlamentarios

ustedes el debate sobre el futuro político de las comunidades autogobernadas está de plena actualidad en todos los ámbitos sí

se encuentra en plena ebullición como decía en europa con la referencia clara de la decisión y el acuerdo adoptado entre gran bretaña y escocia

con flandes o en italia con el véneto es el debate que plantea una nueva forma de construir europa

se niegan un debate no solo desde los estados en cuanto a lo que es el proceso de construcción

de arriba a abajo por parte de los estados sino desde los pueblos que la conforman aplicando el principio de proximidad y de subsidiaridad porque desde la cercanía se responde de forma más eficaz a las demandas y necesidades de la ciudadanía también en el estado español se debate en torno a las virtudes y deficiencias del modelo autonómico vigente se discute sobre los cambios estructurales que han de introducirse en el mismo esta semana como usted bien recordaba hemos asistido al debate sobre la solicitud del parlamento de cataluña de la competencia de la delegación de la competencia para la convocatoria de una consulta sobre su futuro político un debate

pero que ha quedado totalmente abierto desde el punto de vista político la situación vasca es distinta porque acabamos de salir del túnel negro del terrorismos que ha condicionado y condiciona señor urizar

vivimos una situación distinta porque nos corresponde tejer una nueva convivencia comenzando por la propia normalización de las relaciones políticas como es obvio que sucede todavía a día de hoy entre las formaciones políticas la situación en relación a cataluña es distinta pero no distante todo lo contrario los territorios vascos articulados en tres ámbitos políticos administrativos señor urizar configurados en la comunidad autónoma vasca

han recorrido su propio camino hacia el autogobierno un camino jalonado de experiencias políticas diversas

y democrática de su identidad singular una identidad que no busco para el año dos mil veinte sino que pretendo que se mantenga en el año dos mil veinte

tal y como queda recogido en nuestro programa de gobierno así como también las formaciones políticas que participamos

la aprobación y desarrollo de la comunidad autónoma de euskadi constituye un claro ejemplo del recorrido realizado especialmente desde la aprobación del estatuto de gernika cuyo desarrollo pleno

durante este tiempo se han producido graves incumplimientos y disfunciones su origen es diverso pero la actitud constante ha sido la aprobación por parte del estado español de normativa de carácter básico que ha ido limitando y reinterpretando el núcleo competencial genuino pactado y refrendado por la ciudadanía vasca en mil novecientos setenta y nueve

reiteradamente ratificado por esta cámara muy especialmente desde el año noventa y tres el parlamento vasco viene reclamando la asunción y aplicación por parte del estado

sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta integral satisfactoria beraz urizar jauna euskal autogobernuak ez du inongo aldaketarik

y partimos de unas bases sólidas el principio democrático más básico exige dotar a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía de un valor normativo relevante a mi juicio la afirmación de que la sociedad vasca constituye un pueblo con derecho y capacidad para decidir sobre su futuro una sociedad

sea respetada la constatación de que la sociedad vasca está conformada por identidades plurales que deben convivir desde el respeto mutuo en un escenario democrático la opción por el diálogo como método de resolución de los conflictos el diálogo y la negociación propiciando

o en su defecto en el respeto al posicionamiento mayoritario de la sociedad representada también en esta cámara el respeto al principio de que todo proceso democrático requiere inclusión frente a exclusión requiere igualdad de condiciones

hemen eusko legebiltzarrean hain zuzen ere durante los últimos treinta y cinco años hemos vivido insisto modificaciones de calado de gran calado en el entorno económico en el entorno cultural en el entorno social en el entorno institucional sin embargo

y en esto quiero hacer énfasis el último intento fue la propuesta de nuevo estatuto político aprobada hace diez años en esta misma cámara y no admitida a trámite en el congreso una actitud que se ha revivido esta misma semana cuando una propuesta aprobada por la amplia mayoría de un parlamento

hoy insisto señor urizar en euskadi vivimos un nuevo tiempo y se ha abierto la puerta

un nuevo pacto político un nuevo estatus jurídico político para el autogobierno vasco y para el futuro de nuestro país y el primer paso ha sido la constitución de la ponencia parlamentaria esta ponencia nace con la aspiración de poder alcanzar el máximo consenso posible desde lo que es la pretensión del grupo que sustenta gobierno en este caso el gobierno participa de la necesidad de buscar un nuevo acuerdo un acuerdo sustentado insisto en el diálogo como herramienta básica de definición

jurídico política en la que se respeten los derechos de la mayoría y de la minoría un acuerdo que conduzca de la unilateralidad y la subordinación por la vía de hecho

un acuerdo en el que se preserve la convivencia de identidades y realidades nacionales distintas el resultado de esta ponencia que se ha constituido no está escrito todavía sus resoluciones deberán dar lugar a propuestas y textos concretos y me ha preguntado usted

el gobierno vasco ha mostrado su disposición a contribuir en la redacción de los textos concretos que deriven de lo aprobado en la ponencia en caso de que los grupos parlamentarios

y todo ello debe ser posible en un marco que tiene que ir mucho más allá de una simple declaración en el congreso en la que se proclama que quien esté interesado en cambiar la constitución lo pueda hacer ha sido lo que he visto estos días pasados un brindis al sol

ha sido un brindis al sol porque hace muy poco tiempo los hechos contradijeron estas palabras

se modificó la constitución para incluir en la misma la exigencia del cumplimiento del límite de déficit y en ese momento de modificaciones express

propuso una reforma constitucional de mayor ambición y calado un cambio que abriera un nuevo tiempo político real con la asunción de la realidad plurinacional del estado quienes ahora dicen estar dispuestos a abrir la puerta entonces demostraron lo contrario porque la cerraron a cal y canto dilatar los problemas no es una solución

solo existen dos alternativas una ya la hemos conocido y es la imposición

diálogo negociación y acuerdo y ahora permítame hablar de sus intenciones de las suyas porque usted me pregunta por las mías y hoy

todas ellas iniciativas que en su tiempo ustedes mismos denostaron y despreciaron espero y deseo que esta vez cambien de actitud y aprovechen las oportunidades

con añoranza en el futuro nuestro objetivo político aboga por la necesidad de un acuerdo incluyente entre las diferentes sensibilidades políticas del país un acuerdo compartido tramitado en las instituciones competentes este parlamento vasco que se someta a la aprobación de la ciudadanía vasca mayoritaria representada en este parlamento vasco

por la sociedad diálogo negociación y acuerdo es la alternativa de futuro

sí gracias presidenta señor lehendakari el pasado día dos de abril

txema urkijo fue destituido por usted debido a discrepancias y diferencias constatadas y observadas en la metodología de trabajo común

según la nota oficial del propio gobierno vasco el propio secretario

aseguró después de la destitución que el cese de txema urkijo como asesor de víctimas no está asociado a discrepancias políticas de fondo sino que tiene que ver con una

el método de trabajo y tampoco por lo tanto con su decisión de ocultar la carta que el miembro de la banda terrorista eta kepa pikabea entregó

este la remitiese a una víctima del terrorismo por lo tanto podríamos estar ante una especie de choque de caracteres lo que ha llevado a la destitución del señor txema urkijo sea como fuera señor lehendakari lo que nos preocupa fundamentalmente de la cuestión

de su gobierno lleva tiempo sin cumplir las funciones que en nuestra opinión debería cumplir según el decreto de nueve de abril del año dos mil trece por el que se establece la estructura orgánica y funcional

a la secretaría general de paz y convivencia le corresponde el diseño e impulso de estrategias y acciones

la dirección y la coordinación de las políticas sobre la atención a la víctimas del terrorismo así como la promoción de los derechos humanos

ni la secretaría general de paz y convivencia ni el gobierno vasco ni usted mismo están liderando nada que se le parezca a lo que debería ser una política contundente para deslegitimar la historia criminal de eta defender la verdad de los hechos ocurridos

la dignidad de la sociedad vasca tanto la secretaría general de paz y convivencia y el propio gobierno vasco y usted mismo se han comportado de manera

a los criminales que a las víctimas han elaborado un infumable plan de paz y convivencia y han pretendido y pretenden diluir el terrorismo de eta es decir han actuado vienen actuando a imagen y semejanza

del partido nacionalista vasco queremos saber si la línea de actuación va a seguir siendo la misma que hasta ahora o si van a corregir su forma de comportarse si van a corregir sus políticas txema urkijo que ha estado trabajando en varios gobiernos durante bastantes años y que durante el último año ha trabajado silenciosamente para su gobierno señaló tras su destitución que al gobierno de urkullu le falta hacer

y añadió que el equipo nunca ha funcionado es decir que durante todo este tiempo el equipo no ha funcionado o no ha hecho lo que debía hacer en nuestra opinión lo que las víctimas del terrorismo merecen no es un gesto por parte del gobierno vasco sino que el gobierno vasco cambie profundamente su política

que abandone definitivamente la equidistancia que se preocupe más de las víctimas del terrorismo que de los presos de eta y que ayude a elaborar un relato verdadero de los hechos ocurridos es más no es que sean las víctimas del terrorismo las que merezcan sino que toda la sociedad vasca lo merece según informe reciente del instituto vasco de criminología el sesenta y dos por ciento de las víctimas responde que temen la impunidad de los terroristas es un dato por lo que se ve esta no es una preocupación solo de upyd

de las víctimas porque observan el gobierno vasco que tienen

preocupadas y por eso temen la impunidad de los criminales ustedes abandonado a las víctimas del terrorismo en realidad nunca han estado cerca de ellas muchas de ellas señor lehendakari están viendo con dolor su insensibilidad con ellas muchas de ellas señor lehendakari están viendo con dolor esta etapa de descomposición de la banda terrorista por qué porque temen la impunidad de los criminales

se convierta en victoria política de sus representantes usted y su gobierno son responsables de la desazón de las víctimas del terrorismo y

ustedes son los responsables una mayoría de víctimas no se siente bien tratada por las instituciones y no cree que se haya producido

a su familiar señor lehendakari qué piensa de todo esto cómo va a actuar en el futuro igual que hasta ahora

para que siga aplicando una política equidistante y alejada de las víctimas del terrorismo las víctimas del terrorismo van a seguir estando marginadas fuera de su agenda política lo cierto es que las víctimas del terrorismo abandonadas su política da la espalda a las víctimas del terrorismo y no pretende deslegitimar la historia criminal de eta es más pretende

parece que usted ya ha elegido a aintzane ezenarro así lo hemos leído en los medios luego lo confirmará el tema y el asunto es que usted tiene no solamente que elegir bien

las políticas que va a aplicar a partir de ahora tiene que dar la vuelta a las políticas que ha venido aplicando hasta ahora durante este y medio por lo tanto no se trata solo de nombres que también sino sobre todo de políticas y que las víctimas del terrorismo se sientan cercanas a la política

usted debe aclarar si realizará la misma política contemporizadora que ha venido realizando con él o si va a comenzar a atender a las víctimas del terrorismo como merecen si va a seguir prestando más atención a los presos de eta que a las víctimas si va a seguir prestando más atención

que a las necesidades de las víctimas si va a acercarse a ellas o no o si va a mantenerse alejado de las víctimas y de sus necesidades si va a seguir siendo más duro con el gobierno de españa que con la izquierda

si va a seguir siendo más duro con los partidos políticos democráticos presentes en esta cámara o con la izquierda usted y jonan fernandez dicen que las víctimas están arropadas pero ellas dicen que no lo están y yo añado que usted y su gobierno

que de los partidos políticos democráticos es en nuestra opinión un hecho evidente por todo ello le interpelo para que explique cuál será la situación de la secretaría general para la paz

después de la destitución del asesor de víctimas del gobierno vasco y cuál va a ser la política que va a aplicar a partir de ahora si va a seguir la actual o si va a cambiarla
para atender como merecen a las víctimas del terrorismo eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro de verdad me pregunto si tiene mucho sentido que salga a responderle

todos los días de la legislatura pudiéramos estar debatiendo sobre esta cuestión y le demostráramos con hechos no solamente lo que hacemos sino lo que es la trayectoria del partido nacionalista vasco usted al día siguiente vendría a esta tribuna otra vez con el mismo discurso del día anterior

de verdad que espero que se quede con la conciencia tranquila cada vez que interviene en relación a estas cuestiones desde luego el partido nacionalista vasco tiene la conciencia muy tranquila en todo lo que es el cumplimiento de los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos y también de lo que es la atención a las víctimas del terrorismo se lo he dicho en ocasiones anteriores

de sus provocaciones señor maneiro la concepción los contenidos y los objetivos del plan de paz y convivencia no dependen de una persona el compromiso del gobierno vasco con la paz y la convivencia es firme y es completo

es un compromiso del gobierno vasco en su conjunto y del lehendakari en particular

subrayo la atención a las víctimas del terrorismo afortunadamente las políticas públicas de víctimas ni se inician ni se agotan en una persona

como tampoco dependen de un solo partido ni de un solo gobierno son el resultado

representan una determinación que no está en juego ni en discusión ni mucho menos en riesgo señor maneiro en materia de víctimas el plan de paz y convivencia otra cosa es que usted no comparta el plan de paz y convivencia cosa que es muy respetable

es constatable en el propio plan de paz y convivencia y en materia de víctimas el plan de paz y convivencia del gobierno vasco ha llegado para sumar este plan suma porque para empezar incluye todo lo que ya se venía haciendo en la anterior legislatura en esta materia de víctimas

se habían puesto en marcha en anteriores legislaturas el plan ha venido a sumar

porque insisto en que no hay nada que antes se hiciera y que ahora se haya dejado de hacer hablo de hechos y hablo de actuaciones hablo de medidas

no hablo de percepciones trato de ser objetivo aunque entiendo también la subjetividad con que se han abordado estas cuestiones y la subjetividad con la que

en las políticas de víctimas tenemos un compromiso de continuidad con el camino recorrido hasta la fecha sería necesario mencionar muchos nombres propios de distintos gobiernos de distintos partidos

como coparticipes en este camino la política de este gobierno en relación a las víctimas es por lo tanto y en primer lugar deudora del pasado continua

y de una sólida determinación política damos continuidad a una trayectoria y una realizaciones de años y creo importante dejar constancia de una evidencia la atención a las víctimas ha mejorado con el tiempo y lo ha hecho de forma radical lo digo señor maneiro y se lo he dicho anteriormente también

que comenzaron a dar las instituciones públicas y conozco en profundidad la atención y dedicación que hoy se presta a esta materia vuelvo aconsejarle

en aquellos momentos iniciales no había ni secretaría general ni dirección de víctimas ni asesoría personal y eventual de confianza dicho sea de paso que yo no sabía que podría ser un cargo vitalicio

ni consejo de participación de las víctimas ni planes ni proyectos hoy los hay en esta materia hemos crecido y lo hemos hecho desde la convicción

he sido partícipe y testigo en primera persona de acuerdos políticos e institucionales

también en lo relativo a la atención a las víctimas hoy estamos mejor y tenemos que reconocerlo y dar continuidad al camino recorrido el gobierno vasco no se ha conformado

tenemos un compromiso de mejora queremos mejorar el plan de paz y convivencia incorpora nuevas iniciativas de refuerzo y renovación

son nuevas medidas propuestas durante este primer año que ya se venían implementando y que van a seguir impulsándose con más intensidad señor maneiro

contamos con un equipo de trabajo deseoso de mejorar y dispuesto a hacerlo y le pido que lea mejor los medios de comunicación los titulares de los medios de comunicación

hemos adoptado un compromiso de continuidad y también un compromiso de mejora así he aceptado señor maneiro la propuesta de refuerzo por la directora de víctimas y derechos humanos

personas con sensibilidad personas con compromiso personas con trayectoria lea mejor los titulares de determinados medios de comunicación

un compromiso de no utilización ni instrumentalización partidaria de las víctimas no usar ese argumento para pretender obtener réditos electorales

pidió pidió la destitución del señor urkijo pidió la destitución del señor urkijo usted señor maneiro

defendiendo justamente lo contrario amparándose en unas manifestaciones

y la sociedad vasca creo que lo ha percibido lo peor y lo más triste de esa actitud y esa instrumentalización es que a quien principalmente perjudica es a las propias víctimas

contribuye a la revictimización constante de muchas de ellas

de tomar parte en una ponencia de paz y convivencia que está constituida para que cada cosa se trate en su sitio con la reserva

nos reclaman usted habla de gestos yo hablo de consensos yo hablo de compromisos

de las dieciocho iniciativas del plan de paz y convivencia seis tienen relación directa con las víctimas se trata de las iniciativas uno informe de clarificación del pasado

apoyo reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo cinco apoyo reconocimiento y reparación a víctimas sin amparo en la actual legislación dieciséis educación este es el marco de compromisos escritos y recogidos en el plan el trabajo de todos los integrantes de la secretaria general

está vinculado a un compromiso institucional del gobierno vasco con las víctimas un compromiso de pasado sí pero de presente y de futuro

desde hace varias legislaturas vamos a seguir actuando la iniciativa cuarta del plan de paz y convivencia prevé desarrollar dos ejes de actuación complementarios

y reparación a las víctimas del terrorismo que se han desarrollado en las últimas legislaturas y por otra parte se propone la incorporación de nuevos acentos en esta materia

como no dejó de trabajarse hasta el último día de la anterior legislatura señor maneiro en relación con la incorporación de nuevos acentos puedo destacar algo

en el balance de lo realizado este año cabe subrayar cinco hechos con acento propio hecho primero se ha producido un relanzamiento efectivo del consejo vasco de participación de víctimas del terrorismo con una dinámica más intensa en contenidos y en número de encuentros

se ha producido un relanzamiento explícito documentado y consensuado con la comunidad educativa del programa adi adian se ha desarrollado en ese sentido un trabajo de participación

muy positivos hecho tercero con el apoyo del instituto vasco de criminología de la upv se ha desarrollado un proceso de escucha directa a las víctimas mediante entrevistas personales que ha ofrecido conclusiones muy interesantes para el futuro hecho cuarto se ha entregado al parlamento un completo estudio sobre la denegación de las indemnizaciones que corresponden por ley a las víctimas del terrorismo hecho quinto se ha puesto en marcha un estudio sobre atentados no esclarecidos para conocer

qué procesos han seguido y en qué situación se encuentran actualmente este es el primer estudio que una institución pública encarga sobre esta materia señor maneiro
estos son los hechos la mejor prueba de compromiso del gobierno en la atención a las víctimas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

gracias presidenta señor lehendakari yo tengo la conciencia muy tranquila

tiene usted la conciencia tranquila el partido nacionalista vasco puede tener la conciencia tranquila vista su trayectoria durante largos años tiempo durante el cual se ha mantenido absolutamente de espaldas a las víctimas del terrorismo puede el partido nacionalista vasco tener la conciencia tranquila

puntuales el partido nacionalista como tal cómo se ha comportado durante estas décadas de ataques terroristas puede tener la conciencia tranquila yo creo que no la puede tener en absoluto nosotros sabemos

qué es lo que ha hecho el partido nacionalista vasco durante estas décadas y sabemos también qué es lo que cada gobierno vasco durante las últimas décadas ha hecho para defender a las víctimas del terrorismo y para lanzar un discurso contundente en contra de eta sabemos qué es lo que cada gobierno ha hecho y sabemos también qué es lo que este gobierno y qué es lo que este gobierno no está haciendo le parece a usted una provocación las últimas declaraciones de distintos colectivos de víctimas

por la actitud de usted y de su gobierno en relación a políticas relacionadas con las víctimas le parece también una provocación las declaraciones

una provocación sí ya sé que no existen miembros o exmiembros de gesto por la paz que han mostrado en los últimos días por la política del gobierno vasco le parece también esto una provocación ahí están los datos en relación a cómo se sienten las víctimas se sienten abandonadas se sienten preocupadas están preocupadas porque pueda haber impunidad para los criminales no es que lo diga este parlamentario

es que lo está diciendo una mayoría de víctimas lo están diciendo también distintos partidos políticos democráticos habla usted

criticado de manera contundente también no solamente por upyd sino por otros partidos políticos democráticos se lo han dicho ellos usted dice que suma

no suma con los partidos políticos democráticos suma con la izquierda y este plan de paz que es absolutamente equivocado lo que hace es mezclar

con otros asuntos para tratar de diluir el terrorismo de eta esta es nuestra opinión efectivamente y tengo la conciencia muy tranquila es lo que creemos que este gobierno ha hecho durante este

aunque las personas son importantes pero es una política general que se caracteriza por equiparar a las víctimas y a los verdugos es una política que se caracteriza por su obsesión

de eta es una política que se caracteriza por el abandono de las víctimas del terrorismo ellas mismas lo están diciendo se caracteriza por la equidistancia se caracteriza por la inacción para aclarar los crímenes de eta pendientes de resolver más allá de que ustedes hayan encargado un estudio ya hay otros estudios realizados por la vía de los hechos inacción absoluta es una política que se caracteriza también por

y la legitimación de esa vergüenza las víctimas también

o upyd que también las propias víctimas lo dijeron se sienten abandonadas dice que utilizamos a las víctimas siempre se nos ha dicho cosa parecida

con ustedes mayoritariamente con los representantes del gobierno vasco con ustedes están indignadas nosotros no utilizamos a nada ni a nadie damos nuestra opinión siempre lo hemos hecho por lo tanto por todo esto se caracteriza

de este gobierno vasco su política da la espalda a las víctimas del terrorismo y no pretende deslegitimar la historia criminal de eta pretende blanquearla esta política tiene que cambiar esta política tiene que cambiar aunque es evidente siendo jonan fernández el responsable de estas políticas o usted mismo evidentemente tenemos pocas esperanzas de que esta política pueda cambiar va a seguir siendo una política para la equidistancia y para diluir el terrorismo de eta y nosotros saldremos a la tribuna a denunciarlo tantas veces como sea necesaria

mire las palabras de los demás no me parecen no me he referido a provocación por nadie más que usted usted me parece un provocador usted es un provocador y no me va a encontrar por mucho que me duela todas las apelaciones

toda nuestra trayectoria de ciento dieciocho años pero sobre todo en los últimos tiempos desde el nacimiento de eta y desde la actuación

y en relación a las víctimas del terrorismo todo lo que está escrito en las ponencias del partido nacionalista vasco y en un documento

le invito a que se lo lea nuevamente a ver si usted mismo compartiría algunas de las cuestiones en cuanto a principios democráticos y éticos

su posición ante alguna de las cuestiones que usted una y otra vez de manera reiterada plantea señor maneiro yo le he hablado de la continuidad y mejora de nuestra actividad le he hablado

cinco hechos objetivos objetivos cinco hechos que son también gestos a continuación presento los proyectos inmediatos que serán también entre comillas gestos

en la previsión de nuevas actuaciones para los próximos meses cabe destacar dos iniciativas que están en fase de diseño

con cada víctima para escuchar y responder mejor a sus demandas el objetivo es profundizar en la colaboración personal con las propias víctimas y atender en mayor medida

en los procesos de memoria y de construcción de la convivencia mediante la puesta en marcha de grupos de diálogo en este conjunto de compromisos hechos y proyectos inmediatos se sitúa el trabajo de la secretaría general de paz y convivencia y de su dirección de víctimas y de derechos humanos hablemos ahora de lo que usted denomina gestos señor maneiro lo más fácil y menos comprometido es hacer un gesto sí usted hacía referencia a las palabras del señor urquijo que urquijo se planteaba

entiendo que el señor urquijo formaba parte del gobierno de urkullu por lo tanto hablo de los gestos en ocasiones se hace de cara a la galería para quedar bien muchas

le pediría que matice y que precise de qué víctimas habla porque hablar de las víctimas en general me parece muy arriesgado y muy delicado en nuestro caso no queremos en todo caso que el gesto anteceda a los compromisos los hechos y los proyectos queremos que el gesto sea su consecuencia

he participado y mi grupo ha participado siempre en el día de la memoria lo hemos hecho sumándonos a un muy amplio consenso este año también hemos celebrado este día de la memoria pero este año señor maneiro usted no ha querido participar en ese gesto usted no ha querido participar en ese gesto que recuerda a todas las víctimas

que la sociedad respira aliviada y mira a un nuevo futuro de convivencia ahora parece que para algunos como usted es el momento de acumular inconvenientes negativas y problemas entiendo que es tarea de la oposición tratar de desgastar al gobierno que puedo entender que se utilice cualquier asunto con ese objetivo pero sin embargo me cuesta mucho aceptar que se siga utilizando a las víctimas como un argumento de ataque como no comparto esa actitud

para reiterar una invitación me gustaría abrir un diálogo en un espacio constructivo y alejado del rifirrafe cotidiano me gustaría invitar a todos los grupos a propiciar un espacio de diálogo y reflexión compartida hablemos en serio de los compromisos de hechos de proyectos y también de gestos los podemos decidir conjuntamente los podemos compartir tenemos a nuestra disposición

con rigor y con la voluntad compartida de dar una nueva oportunidad a la convivencia tal y como la sociedad vasca nos está demandando a todas y todos los responsables políticos institucionales señor maneiro insisto creo que el mejor gesto que podríamos hacer entre todos es también el que usted podría hacer

parlamentaria de paz y convivencia donde podamos tratar de estas cuestiones con absoluta discreción y con espíritu constructivo por qué no lo hace le invito a ello señor maneiro yo estoy dispuesto eskerrik asko

señora arrondo el gobierno ha asumido su responsabilidad cuál es la responsabilidad

condiciones plantear medidas y poner en marcha los planes estratégicos necesarios para apoyar la reactivación económica y facilitar el empleo pero dicho esto le diré también con toda claridad que el empleo ni en euskadi ni en europa ni en ningún país del mundo se crea por decreto señora arrondo

y lo saben todos los ciudadanos y ciudadanas de euskadi sabíamos

iban a ser los años más duros de la crisis económica que venimos padeciendo desde hace más de un lustro no lo hemos ocultado no hemos engañado las perspectivas económicas empiezan a vislumbrar síntomas de esperanza pero esos síntomas

lo digo señora arrondo y este es el principio de realidad el principio de realidad de la actuación en política por lo menos el de este gobierno que lidero esta es la cruda realidad que viven todos los días nuestras empresas y los trabajadores y trabajadoras vascas si no tenemos una economía competitiva si no creamos nuevas empresas si no fomentamos la internacionalización si no apoyamos la innovación

o propaganda y si no somos capaces de realizar un esfuerzo conjunto para favorecer el clima laboral y el diálogo social

posiblemente todos los debates y las interpelaciones parlamentarias serán desgraciadamente en vano me pregunta por las medidas que ha adoptado este gobierno pues precisamente estamos poniendo en marcha todas estas iniciativas que un gobierno debe poner en marcha y debe adoptar para coadyuvar en la reactivación de nuestra economía y

ez duzue nahi aldatu segi beraz temati zuen kontraesanekin señora arrondo nos preocupa la situación actual y estamos trabajando para cambiarla esos sí sin demagogias me habla usted de un gobierno sin estrategia y sin rumbo para salir del agujero me lo dice usted

cuando usted ostenta la representación de una fuerza política que en las labores de oposición no ha presentado ningún proyecto alternativo por mucho que usted diga lo contrario

públicamente de no tenerlo y de no ser necesario desde su responsabilidad de gobierno en gipuzkoa

quien con el apoyo a los presupuestos del territorio de gipuzkoa

así que permita que le diga que este gobierno tiene proyecto para la reactivación económica que tiene un programa de gobierno con más de seiscientos veinticinco iniciativas que están en marcha que este gobierno ha aprobado un programa marco para la reactivación económica

que este gobierno ha presentado un plan de empleo dotado de setecientos setenta y cinco millónes de euros que este gobierno acaba de aprobar

nuestra competitividad y en definitiva el empleo que este gobierno ha reforzado su apuesta por la innovación

y programas de apoyo a la industria que este gobierno ha firmado un acuerdo con las sociedades

para facilitar seiscientos millónes de avales y prestamos a las pymes beraz arrondo andrea

esan duzu no se crea empleo por decreto hoy se está destruyendo empleo por decreto en la administración pública

por decreto en la administración pública si hay voluntad para ello se puede repartir el empleo se puede negociar con la parte social para mejorar los salarios

incrementar todas las medidas que den cobertura a las personas que viven en esta sociedad hori ere guzti horrek zerikusia dauka ekonomiarekin

arrondo estoy convencido de que sin la apuesta en marcha de los programas y de las inversiones que contempla el plan de empleo del gobierno

si hemos cerrado dos mil trece con menos personas inscritas en lanbide que las que había al cerrar dos mil doce es porque hemos adoptado medidas si tenemos una

de la tasa española y permítame la comparación señora arrondo es entre otras cosas porque no estamos con los brazos cruzados esperando a que pase la tormenta nos hemos remangado

datos que han sido remitidos a este parlamento y que por lo tanto son conocidos también para usted señora arrondo según el informe enviado el trece de marzo al parlamento con solicitud de comparecencia del propio consejero a lo largo del año dos mil trece se han invertido solo en programas de choque en favor del empleo doscientos cuarenta y cinco millónes de euros

fomento de pequeñas y medianas empresas emprendimiento empleo juvenil formación para el empleo

y programas de rehabilitación de viviendas y otras infraestructuras públicas esta inversión pública de doscientos cuarenta y cinco millónes de euros y la inversión privada inducida generada que ha ascendido a otros cuatrocientos ochenta y siete millónes de euros ha posibilitado la creación

ha posibilitado el mantenimiento de cuarenta y seis mil empleos especialmente en las pequeñas y medianas empresas ha permitido mejorar la empleabilidad

gracias a los programas de fomento capacitación y formación programas que se han desarrollado especialmente entre el colectivo juvenil y en el colectivo de personas

euskal enpresetan lana egiteko esto es lo que hemos hecho no estamos satisfechos pero vamos a seguir haciendo y vamos a seguir en el empeño vamos a invertir

en colaboración con los ayuntamientos programas de formación a personas desempleadas con compromiso de contratación por programas de contratación a personas jóvenes desempleadas en centros de empresas vascas en el exterior y vamos a aprobar la convocatoria a ayudas a centros especiales de empleo

estos son los datos estos son los resultados y estas son también las iniciativas no estamos bien se lo acepto pero estoy convencido de que sin estas medidas puestas en marcha

guztioi señor lehendakari señores consejeros señora consejera

lo que sucede es que los últimos acontecimientos creo que

esta interpelación y es por el motivo por el cual la he presentado desde luego sin ánimo de repetirme

como ustedes saben las ciudades que son designadas como capitalidad cultural europea suelen aprovechar por lo general suele ser la tónica habitual esta oportunidad para cometer diversos proyectos estratégicos

de desarrollo cultural que aportan cohesión social también y que aportan algo importante como es la conciencia europea no en vano uno de los objetivos

a la hora de establecer estos premios es el de resaltar

es promover un mayor conocimiento mutuo entre los ciudadanos europeos y es favorecer también la concienciación sobre la pertenencia a una misma comunidad europea

lo recuerdo porque no es una cuestión menor para lo que ahora comentaré es decir a través de la cultura de la creatividad de la innovación también aplicada a la cultura abordar los grandes retos de transformación de modernización de convivencia

también especialmente son necesarias seguro que en eso coincidimos todos una vez designada san sebastián

como ciudad capital europea de la cultura en dos mil dieciséis nos encontramos por tanto ante una oportunidad para ser mejores a través de la cultura y de la creatividad una oportunidad también y hay que decirlo económico una oportunidad de desarrollo un escaparate ante europa y el mundo con el que demostrar esto que tanto décimos los vascos que somos como es profesionalidad capacidad

la pregunta que cabe hacerse a día de hoy es lo estamos consiguiendo estamos siendo capaces de proyectar y de demostrar que los vascos tenemos capacidad de hacer y que somos profesionales

el proyecto en concreto donostia san sebastián dos mil dieciséis está siendo capaz de transmitir y de proyectar todo eso

y ese objetivo necesario también de proyectar lo mejor de euskadi lo mejor de los vascos a través de una oportunidad magnífica como es esta de la que se va a beneficiar se debería

se deberían de beneficiar el conjunto de los vascos y el gobierno vasco

en el desarrollo de este reto o en la consecución de este reto mejor dicho es parte fundamental en el desarrollo de este proyecto existe un patronato

con otros dos lo conformaron al que luego se incorporó el ministerio de cultura

la realidad señorías es que las cosas no van bien

las cosas se están haciendo rematadamente mal la gestión del proyecto es errática y a día de hoy a día de hoy

del dos mil dieciséis no existe proyecto cultural

el diecisiete de junio del año dos mil trece que ya ha llovido algo un comité evaluador de la comisión europea

acudió a san sebastián visitó la ciudad de san sebastián para conocer el desarrollo de los trabajos y emitió un informe qué dijo

dijo que había un gran retraso sobre el calendario previsto dijo que faltaba estabilidad y por lo tanto pidió estabilidad en el equipo gestor del proyecto y subrayó la necesidad de contratar a alguien con un perfil de probada experiencia a la hora de dirigir programas internacionales de similares dimensiones

hoy se suceden las dimisiones en el equipo gestor

sucesivamente no hay la más mínima estabilidad en el equipo gestor

se han producido recientemente no hay transparencia en la gestión

en la gestión y como muestra de la falta de transparencia les diré que nosotros en el grupo municipal

pidió algo básico el pasado diecinueve de marzo

de la oficina y el número de personas que trabajaban en la oficina y si me permiten la expresión

en la oficina de la capitalidad y hablaba también de falta de profesionalidad porque lo que se está transmitiendo es una especie de amateurismo

falta de conocimiento o en cualquier caso falta de empuje pero es más

no hay el concurso de ninguna entidad privada a día de hoy a año y medio de la celebración del inicio del año dos mil dieciséis

porque oiga si usted llama a puertas y le dicen que no pero es que no lo han buscado los gestores los responsables últimos

y ahora se nos dice ahora a año y medio que pretenden contratar a una agencia para la gestión de patrocinios cito textualmente

a año y medio de la celebración de este importante evento y así estamos

dos mil quince dos mil dieciséis con lo que eventuales patrocinadores de la misma obtendrían beneficios fiscales lo cual por otra parte

no hay proyecto cultural lo único que tenía que hacer el equipo gestor es desarrollar un proyecto cultura y a día de hoy no hay ni tan siquiera un borrador

que a veces parece una memoria económica otras parece un borrador de presupuestos

y saben qué dice ese borrador

de qué proyectos habla señor lehendakari me parece especialmente grave y yo sé y

saben qué dice de qué proyectos culturales habla habla

habla de la instalación de iluminación alternativa en el espacio público habla de recorridos para reflexionar en torno a la velocidad del bienestar habla de modelos alternativos en lo que al bienestar se refiere habla del modelo cooperativista vasco desde una perspectiva artística habla de formas alternativas de gastronomía

habla de proyectos encaminados a analizar formas alternativas de pensar y vivir las fronteras habla de formas alternativas

formas alternativas de actuaciones que permitan conocer las teorías feministas

habla de desarrollar un modelo alternativo de pensar y vivir la sexualidad

desde igeldo hasta la isla de santa clara habla de un puente tibetano

esto está en esta cosa que parece un borrador de todo lo que antes le he dicho es preocupante

pero es que ustedes señora consejera y estoy seguro que con buena voluntad

todas y cada una de las decisiones que se han adoptado en el patronato de la fundación todas y cada una de las decisiones y estoy seguro que desde la buena voluntad

desde su responsabilidad desde la responsabilidad colegiada pero importante responsabilidad que tiene el gobierno vasco en este despropósito en el que se está convirtiendo la gestión

qué van a hacer para intentar corregir este camino hasta ahora probablemente haya habido más buena voluntad

yo creo que la buena voluntad ahora se tiene que traducir en determinación para corregir este despropósito en el que nos ha llevado

donostia dos mil dieciséis no es un proyecto de los partidos políticos ni de las instituciones

el que está en juego sino el prestigio y la imagen de donostia de euskadi y de toda la ciudadanía

que debe servir de ayuda para unir y no para distanciar a la sociedad ahora más que nunca necesitamos sumar avanzar y alcanzar un amplio consenso a favor de este proyecto una implicación clara y decidida por parte de las instituciones los agentes sociales y políticos a favor de la capitalidad europea donostia dos mil dieciséis un consenso imprescindible que brindará la fuerza y energía necesarias para alcanzar la necesaria estabilidad del proyecto

debemos ofrecer tras el impás provocado por el inesperado abandono del proyecto

asumiendo la realidad y buscando soluciones con el único objetivo de alcanzar el éxito del proyecto tenemos año y medio por delante

caer nuevamente en los errores cometidos de este modo el patronato ha adoptado ya una serie de decisiones que permitirán avanzar con paso firme en esta nueva etapa en primer lugar se ha abordado la reorganización de la dirección de la fundación

como todos saben el patronato ha decidido de forma unánime designar una dirección técnica transitoria

hasta el nombramiento de una dirección general definitiva de consenso una decisión que fue previamente contrastada con el equipo técnico de donostia dos mil dieciséis

dirección temporal está compuesto por el coordinador de proyectos culturales

cuenta además con el asesoramiento de txuri aranburu responsable de la comisión de coordinación del ayuntamiento de san sebastián para el proyecto donostia dos mil dieciséis y de santi eraso asesor de la fundación y director cultural en la fase de candidatura de proyecto este es el equipo que subrayo de manera temporal

en nuestras manos está animar y apoyar a sus integrantes en la labor nada fácil que se les ha encomendando

su imagen y su labor el patronato

y de consenso para ello el comité ejecutivo de donostia dos mil dieciséis ha solicitado de manera oficial

un análisis de las posibilidades existentes para llevar a cabo la selección y contratación del necesario equipo directivo en el menor plazo de tiempo dentro del marco legal vigente

creo que a través de los medios ya se han planteado las distintas alternativas pero en todo caso estamos a la espera de que el análisis jurídico oficial sea presentado ante el comité ejecutivo

con el único objeto de configurar el equipo directivo que la capitalidad donostia dos mil dieciséis necesita y merece

credibilidad y estabilidad al proyecto la segunda de las decisiones adoptadas por el patronato responde a la necesidad de socialización del proyecto

resulta evidente que hasta el momento no se ha llevado a cabo una adecuada política de comunicación no voy a volver a incidir en todos los comentarios que usted ha hecho de cuál es el pasado del proyecto estamos mirando hacia el futuro no se ha sabido transmitir la esencia del proyecto

y en consecuencia no se ha conseguido trasladar la debida ilusión a la ciudadanía sin embargo no es justo

porque lo cierto es que detrás de todos esos titulares detrás de todas esas declaraciones y críticas vertidas y detrás de las dimisiones producidas existe una ingente labor que sería una lástima desaprovechar

estos días además de las críticas de los partidos políticos principalmente hemos tenido ocasión de escuchar y recibir numerosos mensajes de apoyo al proyecto de ganas de seguir adelante

que este proyecto salga tanto desde el ámbito cultural como el social

lo que está aquí en juego no es un partido político ni el ayuntamiento está en juego la imagen de euskadi y tenemos que trabajar todos por ello sabemos

convencidos de que lo podemos sacar adelante estamos a tiempo de conseguir que la ciudadanía se implique se involucre y recupere la ilusión de un proyecto que merece la pena

todos los esfuerzos hoy y que tendremos que seguir haciéndolo mañana eskerrik asko uriarte andrea